si las cifras no me fallan estaríamos hablando ya de seiscientos setenta credenciales entregadas siendo usted consejera de seguridad señora beltrán de heredia a otros tantos y tantas ertzainas que van reforzando la

apuesta estratégica de su departamento desde que usted tomó posesión del mismo

usted se comprometió a mejorar la coordinación y la colaboración con los ayuntamientos vascos entre otros aspectos para profundizar y homogeneizar la formación de las distintas policías en euskadi en el propio plan de seguridad pública de euskadi dos mil catorce dos mil diecinueve se recoge el compromiso de establecer un programa de alianzas policiales para entre otras cosas

con los ayuntamientos lo que en el caso de los ayuntamientos que disponen de servicios de policía local

para la utilización de bolsas de trabajo comunes y también para la gestión de procesos selectivos unificados para la contratación del personal de sus respectivas policías locales y que se está haciendo con éxito en la academia de arkaute estos compromisos explicitados en el plan general de seguridad pública de euskadi con sus objetivos e indicadores

reguladora de las bases de régimen local la ley establece que la cooperación económica

y las comunidades autónomas tanto en servicios locales como en asuntos de interés común se desarrollará con carácter voluntario bajo las formas y en los términos previstos en las leyes

en el fondo señora consejera estamos hablando de poner en marcha mecanismos de cooperación de coordinación y de colaboración entre las administraciones para facilitar las cosas y hacerlas mejor algo en definitiva que la ciudadanía nos exige cada vez con más rigor y cosa que está bien por cierto en este caso hablamos de materias relacionadas con la seguridad policial y la seguridad pública horrexegatik guztiagatik sailburu andrea galdetzen dizugu

laurehun ertzaingai berri hautatzeko deialdia zabalduko dugu lo importante por tanto es mantener este ritmo planificado constante para

con el objetivo siempre de mantener la estructura de personal necesaria para atender las necesidades de seguridad policial de euskadi en todo aquello que nos concierne

lana el veintisiete de julio procederemos por tanto al reparto de credenciales a ciento dieciocho agentes de policía local que han completado la formación en la academia de

proceden de la primera convocatoria conjunta para policías locales de doce ayuntamientos liderada por el departamento y la propia

realizado por el ayuntamiento de bilbao y vienen a completar la entrega de credenciales a treinta y ocho agentes de cuatro municipios gasteiz tolosa

por tanto se puede decir que la actividad de la academia vasca de policía y emergencias está siendo intensa

ciento cincuenta y seis agentes de policía local y más de ciento noventa interinos

la convocatoria del nuevo proceso unificado de selección de policías locales se han interesado ya veintiséis ayuntamientos muchos de los cuales ya han firmado la encomienda de gestión

funcionarias de policía local a lo que habría que añadir los cuatrocientos

estamos por tanto consolidando un modelo integral de policía vasca y también el sistema de seguridad pública de euskadi se trata desde el máximo respeto a la

de cooperar en el marco de la seguridad pública de euskadi helburua zehatza da elkarrekin egin baliabide publikoen erabilera

eso fue lo que se nos dijo pero resulta que nos encontramos a día de hoy que dicho esto hay una investigación

del país vasco en el cual se están investigando en relación con este concurso unas sospechas de prácticas irregulares y de que los pliegos de ese concurso

teledirigidos para que unas empresas concretas y determinadas obtuvieran las mejores puntuaciones y pudieran acceder a ese concurso la gestión de todo lo que ha sucedido desde el punto de vista de la consejera nos parece nefasta

investigar desde el propio departamento no vale decir que no sé

no se ha hecho nada tendría que haber comparecido ante esta cámara tendría que habernos explicado qué es lo que pasaba tendría que haber paralizado el concurso y lejos de haber paralizado el concurso

abierta y está en marcha usted lo publica publica un concurso que está paralizado en el boletín al de unos días de conocerse que se está haciendo

para saber cuál es toda la intencionalidad de esta situación

eta hori da gertatu dena aquellas sospechas que los trabajadores y las trabajadoras nos dijeron que existían y que se nos dijo en aquella comisión que estábamos hablando de cosas extrañas y de que bueno siempre estábamos con la mosca detrás de la oreja y que todo consistía en meternos con el gobierno porque aquello era lo más limpio del mundo

se ha ido a la fiscalía y esas diligencias están abiertas y eso es lo que ha pasado y la pregunta que hacemos a la consejera es qué conoce de esto y sobre todo

no ha paralizado ese concurso no ha abierto una investigación interna no ha venido a la comisión parlamentaria a dar explicaciones

está parlamentaria desde su trabajo de la oposición la que le requiera la que le pida explicaciones

tan importante como un concurso público con apariencia de amaño con apariencia de querer beneficiar a unas empresas concretas y que tiene

del tribunal superior de justicia del país vasco eso es lo que le preguntamos

señora goirizelaia voy a responder a las dos cuestiones que considera claves

la primera respecto a la pregunta que usted me hizo de sí creo adecuada la adjudicación realizada en torno al servicio de justicia restaurativa categóricamente le digo que sí la adjudicación del nuevo servicio de justicia restaurativa se está realizando cumpliendo todos los requisitos

exigidos para la misma y la segunda en relación con los trabajadores y trabajadoras del servicio de intermediación judicial tengo la seguridad de que la mayoría de los trabajadores que hoy están prestando ese servicio

le aseguro que para mí y para todas las personas con responsabilidad en el departamento de trabajo y justicia es una prioridad el mantenimiento del empleo de los trabajadores y trabajadoras por nuestra parte y cumpliendo con lo aprobado en la comisión de trabajo y justicia

con la nueva adjudicataria en este sentido respecto al procedimiento seguido le voy a recordar los aspectos más significativos porque ya se le explicaron en su momento a todos los grupos el nuevo servicio de justicia restaurativa tiene su precedente en el servicio de mediación intrajudicial

las razones por las que decidimos dar el paso de convocar una licitación fueron fundamentalmente dos una que queríamos dar un salto cualitativo incorporando nuevas técnicas

restaurativas con los círculos y las conferencias y la otra cumplir estrictamente con la normativa contractual para ganar en transparencia y control

procedimiento abierto de licitación de acuerdo con esta decisión se dio

tanto técnicos como administrativos pliegos que no fueron recurridos por ninguna empresa un objetivo que nos marcamos a la hora de convocar el concurso fue el de garantizar

logramos conseguir que en la licitación participarán cuatro empresas

ha dicho que en el procedimiento de valoración han prevalecido los aspectos subjetivos sobre los objetivos nada más lejos de la realidad usted ha podido analizar el pliego de

existe uno que es la valoración del proyecto al que se otorgan cuarenta y nueve puntos de los cien posibles en esta valoración no se hace ninguna ponderación global sino que se establecen cuatro subcriterios perfectamente definidos y con su correspondiente ponderación en el expediente de adjudicación que se puede consultar en el perfil del contratante aparece la valoración técnica

proyectos presentados el criterio objetivo es el de mayor ponderación con cincuenta y uno puntos sobre cien el precio efectivamente el criterio del precio no es el único pero convendremos usted y yo que una rebaja del precio de licitación

y son frecuentes como usted sabe las denuncias sindicales por los efectos que las rebajas del precio en las licitaciones tienen sobre los trabajadores y trabajadoras los argumentos que he expuesto son suficientes para desmontar las graves acusaciones que usted ha vertido y demuestran que todo el procedimiento ha seguido

de transparencia libre concurrencia y legalidad tengo que mostrar

comunicación en los últimos días parte de los cuales ha reiterado aquí no es bueno

prejuicios que ponen en cuestión las actuaciones de un gobierno

sepa usted que el departamento de trabajo y justicia colaborará con la fiscalía en todo lo que se le solicite y

lehendakari jauna zer influentzia o cómo afectarán

a usted le parecían buenos los pactos con el partido popular el veinticuatro de mayo

acordaban los presupuestos con rajoy según ustedes lo hacían creyendo que era lo correcto por responsabilidad mirando al futuro

es más hablaban de tener la conciencia tranquila y de no haber pactado esas cuentas tapándose la nariz

y es que usted lehendakari el veinticinco de mayo llegó a firmar literalmente que hay muchos partidos que apoyan a partidos con causas de investigación pocos días antes de que se emitiera la sentencia condenada

pero qué cosas en siete días pasaron ustedes de defender todo lo contrario a defender todo lo contrario y lo decían así con la voz grave

claro es que ya evidentemente era un poco vergonzoso seguir dando apoyo a un partido político

varios meses quién iba a sospechar que dos días después de que se aprobaran los presupuestos iba a hacer pública la sentencia

cuando apoyaron a pedro sánchez en su moción de censura para echar

amigo rajoy decían que era algo meditado que era una cuestión ética

de la estabilidad a la catarsis en una semana es un cambio muy brusco especialmente para un partido de orden como es el suyo

es cierto hace falta una catarsis en política la primera y fundamental no apoyar ni sostener a gobiernos corruptos

es la que pasa por no preguntar qué hay de lo mío cuando está en juego la dignidad de las instituciones

la de no jugar a decir una cosa un día y la contraria al día siguiente como ha hecho usted y su partido en los últimos meses hoy fruto del azar y otro poco

con el diablo su gobierno es más débil y lo es porque en esta cámara no tienen mayoría y han perdido ese socio

pero que en el fondo les marcaba la agenda se avergonzaban del pp de su última relación con ellos pero han sido ellos los que han dictado la rebaja de impuestos a las grandes empresas hace medio año

eran ellos con los que pretendían pactar la infame reforma de la rgi

ahora que según egibar han incumplido la palabra dada ahora que

sus propuestas porque usted y su gobierno cerraron desde el primer minuto la posibilidad a ningún acuerdo social no hay más que ver

una huida hacia adelante soberanista con bildu y alejarse del psoe del gobierno de sánchez o dejar

qué hará señor urkullu porque nosotros lo tenemos claro seremos exigentes

señor martínez después del refrito de declaraciones

de declaraciones confundiendo lo que es el partido nacionalista vasco con el gobierno vasco en todo caso le recomiendo que le pregunte

mire se ha producido un cambio y espero que resulte positivo

la legislatura estaba agotada y reitero que fue ciudadanos quien lo certificó y también podemos

ahora usted ya no puede seguir mirando los toros cómodamente desde la barrera unidos podemos será un actor clave en relación al efecto positivo negativo o nulo que tengan los propósitos del gobierno español este efecto dependerá también de su posicionamiento no me pregunte solo a mí pregúntese

qué puede hacer unidos podemos para mejorar la situación política en euskadi se ha abierto una nueva etapa y espero una nueva actitud en forma y fondo primero una nueva forma de hacer política asentada en el diálogo con voluntad de acuerdo

y veo una oportunidad al servicio de la regeneración ética y moral y la reivindicación de la acción política especialmente de cara a la generación joven segundo una nueva actitud para encauzar las cuestiones de fondo que demandan compartir diagnóstico

a los retos de futuro que afrontamos cuestiones de estado como avanzar en la igualdad integración europea modelo territorial convivencia educación pensiones servicios públicos esenciales energía medio ambiente o apoyo a la reactivación económica y la generación de empleo

etapa de diálogo para escuchar y ser escuchado este es el principio el reconocimiento de que los problemas políticos tienen que ser resueltos por la vía

oportunidad espero además que el nuevo gobierno español sepa entender mejor los temas compartidos en el programa del gobierno vasco

convivencia normalizada y encuentro social en euskadi temas todos ellos que cuentan con un amplio respaldo en esta cámara

señores consejeros señores parlamentarios esta pregunta va dirigida al consejero de salud pero me alegra que también esté presente el lehendakari y aquí señor consejero señor lehendakari podemos decir claramente que lo que mal empieza mal acaba y que los acontecimientos que se están sucediendo con esta oferta pública de empleo es un suma y sigue

entre ellos los informes jurídicos que sustentan esta convocatoria señor consejero señores del gobierno este grupo los ha solicitado y espero que en breves fechas los tengamos a nuestra disposición

y eso también va para el señor erkoreka qué garantías proporciona el ivap

el ivap a quién contrata para que haga los exámenes a personas de otras comunidades autónomas o a personas de estas comunidades autónomas

de la propia comunidad autónoma qué papel han tenido los tribunales porque parece que han tenido un papel bastante irrelevante por lo tanto podemos decir que se ha articulado un procedimiento sin las debidas garantías

a la vista están los resultados que apuntan claramente a que ha podido o que hay indicios claros de filtraciones esto es un suma y sigue hoy nos hemos encontrado también que aquí hay que decir que su directora general de osakidetza faltó a la verdad señor consejero cuando decía que ningún alto cargo de osakidetza ni del ivap participaba en los tribunales y hoy hemos conocido

qué va a hacer usted con estos tribunales señor consejero qué va a hacer

qué decisiones va a tomar a tenor de todas las decisiones que estamos conociendo no me voy a referir a las gráficas creo que son conocidas a la carta del miembro del tribunal de angiología y cirugía vascular que obviamente habla de solo cinco aprobados y cuatro casualmente

en cardiología veintidós participantes sacaron el máximo de puntuación es decir demasiadas sospechas

me voy a centrar en la reacción del consejero de este gobierno tarde y mal claramente sobrepasado por los acontecimientos

general aparece el lunes a la tarde en una rueda de prensa después de que salimos los grupos de la oposición en esta cámara y después de que salen también los sindicatos usted ha sido sobrepasado por los acontecimientos y además se ha tenido que desdecir en las propias manifestaciones que dijo el lunes el miércoles que por cierto

usted estuvo la directora general de osakidetza con el director de asistencia sanitaria

y que no se iban a paralizar las pruebas pues el miércoles ya tenemos denuncias y se han paralizado pruebas me quedo aquí señor consejero pero a ver qué decisiones va a tomar usted en el futuro que sería bueno conocerlas

de las presuntas irregularidades que se están denunciando le garantizo que somos los primeros interesados en aclararlas más allá de la utilización políticas que se pueda hacer o que se está haciendo de esta situación

no deja lugar a dudas mire estamos en política y por lo tanto no voy a entrar en las formas y argumentos que cada uno utiliza

dudas obscenas sin ninguna prueba de cargo dudas obscenas pero desde luego

es algo tan serio como el empleo estable de las personas en una institución pública y la reputación del servicio de salud y su partido

para poner aquí las palabras que usted le ha puesto su interés por la transparencia de la ope no es mayor

o el departamento de salud que lleva este consejero le garantizo también que somos los primeros en que esta cuestión

y si hay responsabilidades que se depuren señora garrido a ver si le suena que se depuren este tema no tiene dobleces si usted o alguien

o ante la fiscalía para su investigación no tenemos nada que ocultar mientras tanto osakidetza sigue trabajando para velar por la objetividad la transparencia y la adecuación

efectivamente se han abierto varios expedientes para investigar aquellas pruebas que han levantado más controversias o en función del tiempo transcurrido han

se ha dado a conocer que se va a realizar una análisis exhaustivo

de todas las pruebas de la ope por una entidad independiente una vez concluido el análisis si se demostrará que se ha podido cometer alguna infracción se canalizará por la vía administrativa o judicial según se corresponda y se tomarán las medidas oportunas los tribunales de osakidetza

las mismas personas no físicas pero sí en composición en todas las ofertas públicas que ha habido
en los treinta y cinco años de osakidetza señora garrido cuando usted las apoyaba también eskerrik asko darpón jauna

en que no había denuncias y que no iba a paralizar la ope cuando dos días después no usted su directora general de osakidetza se tiene que desdecir usted está hoy dispuesto a esclarecer los hechos hasta el final y asumir las responsabilidades que correspondan

sin las garantías procedimentales que a la vista está viendo los resultados y los indicios claros de filtraciones y filtraciones fundadas que ha habido

y actuaciones del ararteko no eche balones fuera señor consejero

si usted es el responsable de haber delegado en el ivap para la realización de esta ope usted es el responsable y a quién ha ido el ivap señor consejero a quién ha ido el ivap dónde están las garantías

deje de dudar planteé evidencias el consejero si por algo se caracteriza es porque siempre asume la responsabilidad y de hecho el lunes

y ahí está escrita y me ratifico evidentemente en función de los pasos que se vayan dando y las evidencias que vayamos teniendo las situaciones pueden ir cambiando mire esta ope está constituida por ochenta y seis tribunales en el que participan

y cuando digo profesionales digo profesionales no cargos políticos trabajadores de la administración pública de la misma categoría que los opositores

en un órgano colegiado velar por la transparencia y llevar a buen fin las pruebas esta ope se ha convocado con todas las garantías

algo de vergüenza al decir eso aquí bien mire los tribunales son independientes y soberanos

confiamos en su profesionalidad capacitación y honradez

a quienes aprovecho para agradecer su esfuerzo lo que no quita como le he transmitido para que estemos analizando con rigor los resultados

no nos temblara el pulso para tomar las medidas oportunas eskerrik asko eskerrik asko

zoragarria dela un gobierno de una composición magnífica

señora ugarte nuestro programa de gobierno aboga por ampliar el horizonte del autogobierno con el fin de ir

arbitrando mecanismos institucionales más eficaces para la defensa del autogobierno vasco en relación a esta materia el gobierno vasco respalda la decisión de este parlamento que aprobó solicitar al gobierno español

para avanzar en la profundización del autogobierno ya reconocido y también para plantear un nuevo escenario de relación con el estado desde el principio de bilateralidad y de reconocimiento mutuo

insiste en emplazar al gobierno vasco para que haga cumplir al nuevo gobierno español las decisiones de este parlamento en relación con el autogobierno pendiente

en este emplazamiento desde el principio de realidad en primer lugar le adelanto mi compromiso institucional de mantener un encuentro con el nuevo presidente del gobierno español para analizar las materias recogidas

además de felicitarle por su nombramiento y el de las ministras y ministros recordar las materias que tenemos pendientes muy especialmente

estoy convencido de que tenemos la oportunidad de abordar estos temas con seriedad y voluntad de acuerdo para encauzar

y dicho esto comprenderá la aplicación de un mínimo de prudencia habitualmente es de cien días para que el nuevo ejecutivo pueda evaluar la mejor forma de abordar las demandas

corta si se circunscribe al qué piensa hacer usted para en realidad yo creo que tenemos que ser más proactivos

la pregunta adecuada en mi opinión sería qué podemos hacer juntos para y creo que debemos pasar de conjugar el singular al plural

que avanzar en el autogobierno y en el cumplimiento del actual estatuto es una responsabilidad que no solo atañe al gobierno vasco es un compromiso compartido por todos los grupos parlamentarios representados en esta cámara

y quizás sería más fácil si todos los grupos que han apoyado la moción en el parlamento vasco trasladan y refrendan conjuntamente como su grupo por ejemplo

en el congreso de los diputados instando al gobierno español a cumplir íntegramente una ley orgánica incumplida desde que fue aprobada y refrendada en mil novecientos setenta y nueve ya que ustedes con sus dos votos han apoyado también la elección del nuevo presidente

esta iniciativa tendría un impacto relevante para facilitar la constitución de un grupo de trabajo bilateral que abordara el informe de transferencias pendientes elaborado por el gobierno vasco informe que este parlamento hizo suyo y que traslade también al gobierno español anterior pero dicho lo cual

sé que la iniciativa que planteo tiene sus complicaciones porque

ahora bien creo sinceramente que es factible el cumplimiento del estatuto porque en definitiva estamos hablando de aplicar el principio de legalidad

responsabilidad y exigencia recíproca entre las partes implica abordar y acordar un procedimiento legal y pactado para garantizar el cumplimiento de las decisiones que se adopten

sumar el principio democrático y el principio de legalidad nuestra obligación como representantes políticos y representantes institucionales es sumar para avanzar es necesario un pacto una convención que desde el respeto

la utilización del principio de legalidad como barrera insalvable para el ejercicio del principio democrático el objetivo es reconocer la capacidad de la ciudadanía vasca

el objetivo es avanzar sin prejuicios ni imposiciones en una convivencia acordada

que cuente con mecanismos que garanticen que los acuerdos alcanzados sean respetados y serán respetados y cumplidos beraz orain

hemen aitortu egin ahal izatea señora ugarte no ponga el carro delante de los bueyes salvo que esté pensando en ir marcha atrás

llegue a un acuerdo en este parlamento a continuación hablamos de los demás ustedes tratan siempre de saltar

para no tener que asumir las responsabilidades que les corresponden en madrid han asumido

al nuevo gobierno español aprobar la moción de censura ha supuesto aprobar la puesta en marcha del nuevo gobierno no han establecido condiciones ni vetos han obrado con la generosidad

esa misma actitud es de aplicación también en relación al futuro del autogobierno vasco y además con las mismas formaciones a las que ustedes han decidido sumar sus votos

y asumir responsabilidades usted sabe que la sociedad vasca demanda un acuerdo amplio y sólido para iniciar una nueva etapa y esa oportunidad

con el nuevo escenario institucional y parlamentario abierto en el estado entiendo que ustedes no han renunciado a nada por apoyar al nuevo gobierno español señora ugarte

en mayor medida en tratar de buscar puntos de encuentro aplicando la misma actitud que aplicaron la pasada semana en el congreso mire yo le he planteado una serie de iniciativas la vía de relación institucional entre el gobierno vasco y el gobierno español la vía de la iniciativa política en el ámbito de las cortes españolas

la negociación de un nuevo estatus partiendo de la ponencia de este parlamento estas iniciativas no son excluyentes al contrario pienso que son vías perfectamente compatibles todos podemos remar en la misma dirección para dar respuesta a esta demanda ampliamente sentida por la inmensa mayoría de la sociedad vasca se trata

entre partidos se trata de actuar con seriedad desde el principio de realidad y tomando como base el principio de legalidad para abordar un proceso de negociación con el estado que va más allá de las transferencias pendientes usted ha hecho mención a una moción en el congreso de los diputados en relación a una competencia

el ofrecimiento de una moción en relación al cumplimiento íntegro

nuestro objetivo ampliamente compartido con la sociedad vasca y en la sociedad vasca es un nuevo escenario de convivencia basado en la bilateralidad el respeto mutuo y el reconocimiento de nuestra identidad nacional desde un marco de solidaridad

relación o hace referencia a un acuerdo el conseguido con trampas porque me he referido a un acuerdo secreto y mientras estamos debatiendo ese acuerdo los grupos parlamentarios

ni los grupos parlamentarios ni los sindicatos ni la sociedad porque ustedes han mantenido en secreto este acuerdo y por tanto un acuerdo parlamentario viciado porque no estábamos en igualdad de condiciones porque no podíamos discutir el fondo de la cuestión

y el fondo de la cuestión es tan malo o peor como que las formas

ratifica ese análisis ustedes dejan en manos de confebask aspectos esenciales de la política del empleo la prospección la orientación la intermediación la formación

aquel dicho de poner la zorra a cuidar las gallinas hoy mismo un destacado representante de confebask

es decir que mantenga los instrumentos con los que la patronal ha desmantelado la negociación colectiva y ha precarizado las condiciones laborales y los salarios ustedes lo que están proponiendo y por eso son acuerdos trampeados aquellos en los que se nos ha privado de información configurar a las organizaciones empresariales territoriales como ventanillas empresariales de empleo promoviendo la colocación de los desempleados a través de un servicio de atención integral

de personal todo ello acompañado de generosas nuevas vías de financiación para la patronal esto es lo que ustedes nos están luego le digo donde luego le digo donde esto es lo que ustedes han estado ocultando a la sociedad y también hace trampa cuando dice que este acuerdo es para crear cien mil puestos de trabajo en todo caso será para gestionar

y no este acuerdo la que podría generar en términos hipotéticos estamos hablando solo de un trabajo prospectivo esto no es un acuerdo

de gestionar las tareas que habrían correspondido al servicio público de empleo de lanbide esto es una privatización parcial de lanbide

lo quieren acordar con nosotros o lo van a acordar con la patronal o nos van a decir como a los sindicatos que podemos firmar aquí realmente nuestro grupo está dispuesto a ser constructivo

ustedes dan cinco pasos hacia la derecha y así es muy difícil encontrarnos

pero si van a acordar con la patronal de forma exclusiva como están haciendo hasta ahora pues entonces evidentemente

que actúe con sinceridad no me venga a mí acusando de acuerdo trampa

se suscribe dicho acuerdo marco tenemos un acto ante los medios de comunicación donde explicamos los puntos que contempla dicho acuerdo señor casanova le pido un poco de respeto cuando explicamos los puntos contenidos en el acuerdo

con toda la explicación en todos los medios de comunicación además de lo que pueda de ser la publicación del acuerdo que el propio gobierno vasco haya hecho señor casanova

en que no tiene otra tercera intervención en este pleno para evitar decir dónde está la financiación oculta para las organizaciones empresariales

insta a los agentes económicos y sociales y al gobierno vasco a adoptar las decisiones que permitan incorporar a las organizaciones sindicales a los órganos de concertación socio laboral

como el gobierno vasco hemos manifestado nuestra voluntad de poner a disposición de la mesa de diálogo social el contenido del acuerdo como uno de los temas a ser contractados para su desarrollo y ejecución en dicha mesa me reafirmo en el compromiso con el diálogo y concertación social y así

casi cincuenta mesas de trabajo y negociación con los sindicatos en el ámbito del gobierno vasco además de los órganos de encuentro y trabajo común consejos de relaciones laborales consejo económico social lanbide osalan

son instrumentos eficaces en la negociación y en la concertación con los sindicatos instrumentos que están activos y que función por lo tanto diálogo social existe y me reafirmo en el compromiso

pendiente todavía de ser regulada señor casanova y nadie está excluido del desarrollo y ejecución de un acuerdo

dar respuesta dar respuesta eficaz a la oportunidad

los compromisos firmados son para

y en este caso el gobierno lo va a cumplir y no utilice como excusa el acuerdo marco cuando usted sabe que la estrategia de determinados sindicatos

ha sido boicotear la mesa desde el primer día antes durante y después del acuerdo señor casanova y antes durante y después del funcionamiento de otros órganos casi cincuenta conozco la denuncia que ha presentado el sindicato y mi voluntad es la de seguir manteniendo esa mesa

buenos días gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías

bien hemos podido ver estos días una colección de actos entre el dos y el siete con homenaje al asesino al miembro de eta

hemos visto actos de exaltación y de homenaje actos exaltación discursos tratamiento

un verdadero gudari una persona maravillosa con compromiso y lucha como todos los militantes de no es pura exaltación actos de homenaje ofrendas florales canticos puño en alto aurreskus aquí y allá

máxima expresión de homenaje en nuestra tierra placas colocadas no sabemos si aún no retiradas vamos a ver el de etxebarrieta es homenaje y exaltación o sea es humillación a la memoria de la víctima del terrorista

es insulto público recordar públicamente la trayectoria de un asesino no es un valor democrático ni constructivo para

recuerde su plan de convivencia y derechos humanos las víctimas declaraban el pasado día dos lo siguiente es calumnioso vergonzoso y sobre todo humillante para las víctimas no damos crédito a que los asesinos se les tributen estos homenajes

y otros homenajes son andanadas contra la línea de flotación de cualquier estrategia de convivencia y memoria de las víctimas

señor lehendakari cómo valora la celebración del homenaje el pasado día dos de junio al asesino miembro de eta

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor barrio el día treinta de enero le respondí a una pregunta similar y le dije y reitero que condeno

enaltecimiento del terrorismo o pueda herir la sensibilidad de las víctimas le dije y reitero que los tribunales determinan la autorización o prohibición de estos actos el acto celebrado en tolosa fue judicialmente analizado y sometido a seguimiento por mandato judicial no se produjo prohibición previa

etxebarrieta fuera abatido en un tiroteo con la guardia civil

crítica de nuestra memoria reciente ese día se puso en marcha la concepción de una eta que ejerció la violencia durante el franquismo y que proseguiría en democracia

las distintas ramas de eta provocaron ochocientos cincuenta y tres víctimas y además ciento cincuenta y cinco personas fueron víctimas de organizaciones ultras o parapoliciales

o del abuso ilegítimo de poder el recuerdo de aquel siete de junio de mil novecientos sesenta y ocho es el recuerdo de un día triste trágico y dramático

cambiar el pasado si pudiéramos volver a escribir nuestra historia corregiríamos la página de ese día no tenemos esa posibilidad
pero una memoria crítica nos permite reconocer lo que no debe volver a repetirse eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias señor lehendakari por la condena pero ahora qué va a hacer es decir no se pueden impedir estos homenajes es decir en cumplimiento además del propio plan de convivencia para que se desarrolle por los cauces que están previstos en relación con las víctimas mire el pleno del parlamento vasco en sesión

aprobó una proposición no de ley donde decía el parlamento vasco manifiesta su rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas

utilizaron o justificaron la violencia dichos homenajes son contrarios a la defensa de los derechos humanos

revictimización de las víctimas es decir está claro o sea no se pueden celebrar no se deben celebrar a reglón seguido la ley cuatro barra dos mil ocho nuestra ley de reparación y reconocimiento de las víctimas del terrorismo dice

velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos adoptarán medidas apropiadas para garantizar

la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito menosprecio

ejemplo puro de lo que fue el acto de etxebarrieta homenaje o concesión pública a terroristas actuarán de manera especial

de una responsabilidad directa de los poderes públicos para evitar estos actos estos homenajes estos actos

y usted redacta el plan de paz y convivencia lehendakari y usted tiene que cumplir la ley cuatro barra dos mil ocho lehendakari usted tiene que cumplir la proposición

cómo va a liderar lehendakari llamamiento

el mandato parlamentario de que se rechacen los homenajes de eta y a sus miembros y el cumplimiento de esta ley cómo lo va a liderar qué va a hacer con esas expresiones anticonvivencia lehendakari

señor barrio la justicia no es un poder público

que los tribunales son quienes determinan la autorización o prohibición de estos actos también el parlamento vasco se ha pronunciado en relación a los recibimientos

del propio parlamento vasco también para participar en ella y plantear sus consideraciones

yo insisto la violencia no es el camino y esta es la conclusión que la memoria critica de la sociedad vasca puede extraer después de cinco décadas

del siete de junio de ayer hace cincuenta años cincuenta años después

los hechos nuestro compromiso esta con las víctimas este miércoles antes de ayer

el derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo un estudio elaborado por la asociación de víctimas del terrorismo para el gobierno vasco espero que como todo informe

en este caso como ha sido encargado a la asociación de víctimas del terrorismo no se ha cuestionado como han sido los anteriores a quienes otorgo la misma profesionalidad

en casos sin resolución judicial completa especialmente en aquellos de muy improbable resolución por el tiempo transcurrido este primer informe aborda tres casos josé antonio pardines joaquín ramos gómez

y un reconocimiento de la injusticia radical e injustificada que sufrió provocada por el terrorismo de eta y haremos un trabajo similar con las víctimas de otros terrorismos en casos

este es el trabajo del gobierno vasco responder con hechos a los derechos de las víctimas y el compromiso con una memoria crítica de lo sucedido eskerrik asko

señoras y señores el tema que traemos hoy aquí no es un tema ideológico ni es un tema sobre el trilingüismo ni es un tema sobre los evaluaciones internacionales

es un tema que nosotros consideramos que es un tema de sentido común como ustedes saben hace aproximadamente un mes los miembros de la comisión de educación

relacionada nuestra visita principalmente con los comedores

de reunirnos con una asociación de madres y padres que engloba con más de una decena de centros de la zona o sea que tienen una cualificación importante y una asociación que se llama elikadura gure ardura y hablaron de lo que sucedía en los comedores escolares lo primero que nos dijeron que les llamaba mucho la atención es el mal comportamiento mal comportamiento que no sucedía ni en el mismo patio de recreo ni en las aulas ni en otros sitios los comedores eran un sitio donde verdaderamente los niños tenían un

excitabilidad muy alto y luego

el ruido nos dijeron que incluso hacían pruebas iban a comer

a los centros y sentados en la mesa uno en frente de otro no se podían escuchar

bueno pues nos pareció un tema muy abordable y entonces empezamos a

y así sabemos que la mayoría de estos centros no todos pero sí la mayoría tienen los suelos de terrazo las paredes de bloque y los techos de cemento y qué sucede esto se hace probablemente por una razón muy loable estos materiales primero permiten higiene porque los suelos de terrazo

y permiten un mantenimiento fácil basta con una mano de pintura sobre el bloque

de que el tema no solamente es grave sino que ha sido tratado ampliamente vamos a ver la organización mundial de la salud nos dice que a partir

a la salud un periodo prolongado de estancia en habitáculos que superan los cincuenta y cinco decibelios afecta a la salud

y la ocu ya en dos mil cinco realizó un informe sobre el ruido en centros escolares

sobrepasaba los cuarenta más o menos que son los recomendados si bien la ley

hasta esos cincuenta y cinco que son la frontera entre la inocuidad y

pero vamos más allá siguiendo documentándonos sobre el tema nos dimos cuenta que la autonomía de cataluña el año pasado

hicieron algo que nos falta a nosotros actualmente que es sonometrías en los comedores cuando están a

y mire los resultados que yo creo que no tienen por qué ser distintos aquí porque estamos hablando de centros de una configuración arquitectónica muy parecida

en un comedor en pleno rendimiento son de ochenta y cinco con picos de cien y les vuelvo a recordar la organización mundial de la salud pone la barrera para la inocuidad en cincuenta y cinco y en cataluña se han hecho sonometrías y el ruido más o menos habitual son ochenta y cinco decibelios y tiene picos de hasta cien

las que voy a dar a continuación que quizá parezca que sobran pero es para hacerles sentir lo que puede ser a ver una centrifugadora

tomado en el punto de origen del sonido es decir no un metro

tiene sesenta y cinco decibelios comerían ustedes con el oído pegado a la centrifugadora sería muy molesto verdad

que no tienen por qué ser diferentes a los nuestros los decibelios son ochenta y cinco

con picos más altos con picos de cien entonces de ahí viene nuestra interpelación a la consejera sobre cómo piensa abordar esto que es un problema que al principio nosotros nos pareció un problema de convivencia pero que según nos fuimos documentando nos dimos cuenta
que es un tema no solo de convivencia sino de salud muchas gracias eskerrik asko bengoechea

a nivel europeo la adopción por parte de la unión europea de la directiva dos mil dos barra cuarenta y nueve del parlamento europeo y del consejo del veinticinco de junio de dos mil dos sobre evaluación y gestión del ruido ambiental provocó una nueva concepción de la contaminación acústica cobrando especial relevancia el ruido ambiental

a nivel de la comunidad autónoma del país vasco la normativa de referencia es el decreto doscientos trece barra dos mil doce de dieciséis de octubre

centrándonos en el objeto de su pregunta el ruido en los comedores escolares es un problema muy común e identificado por el departamento que dirijo en este sentido

de este parlamento con ocasión de la presentación de las iniciativas para una alimentación saludable en euskadi la viceconsejera de administración y servicios del departamento de educación tuvo ocasión de referirse al tema que hoy se nos plantea señalando que el departamento

tanto en la mejora de los entornos físicos en los que se ubican los comedores escolares como en la atmosfera de consumo siendo conscientes de los condicionantes urbanísticos

haciendo unos comedores más atractivos y confortables así y tal y como se detallaba en dicha comisión se actuará fundamentalmente en dos áreas

mediante la realización de mediciones de ruido y en su caso adopción de medidas y por otra parte la de acondicionar los comedores dotándolos de una estética más adecuada al fin educativo que se pretende como punto de partida el real decreto

de dos mil siete que desarrolla la ley del ruido del treinta y siete barra dos mil tres establece los objetivos de calidad acústica en decibelios

fijando como usted ha dicho en cuarenta decibelios el ruido recomendado en las aulas

la realidad no obstante es que muchos de los comedores escolares tienen problemas de contaminación acústica ya que es común que se superen los niveles de ochenta y cinco decibelios como usted ha comentado también de forma más o menos habitual e incluso que se registren picos de hasta cien decibelios para hacernos una idea de lo que estos niveles suponen añadiendo lo que usted ya ha mencionado

el movimiento de las hojas de los árboles veinte decibelios el sonido de una biblioteca estaría en los cuarenta decibelios el tráfico en una ciudad marcaria una media de ochenta decibelios

el ruido está considerado como un agente contaminante y su impacto en la audición la salud y la calidad de la vida

convivir con el ruido resulta una molestia para muchos y pasa desapercibido para otros que no llegan a ser conscientes de los niveles sonoros a los que están expuestos en determinados momentos del día

y según la oms especialmente sobre los niños

el treinta por ciento del fracaso escolar se debe a la inteligibilidad en el aula la contaminación acústica afecta claramente al rendimiento cognitivo

además de ser una posible causa de déficit de atención ansiedad y falta de motivación concretamente en los comedores escolares se registran los niveles más altos de ruido de toda la jornada debido a la acumulación de alumnos en un solo espacio

en las aulas pero también a la propia actividad normal del comedor que es el per se generadora de ruido movimientos de platos bandejas mobiliario

en primer lugar y sin lugar a dudas actuando sobre el espacio físico y en paralelo y no menos importante mediante la formación para la concienciación y la sensibilización respecto al problema dirigida tanto a los adultos como a los alumnos

el departamento tiene perfectamente identificadas las medidas a tomar

desde el servicio de prevención se realizan las tareas y funciones adecuadas tanto de asesoramiento y coordinación como de seguimiento y evaluación de las medidas correctoras que se adoptan para conseguir

de su intervención porque la verdad es que incluso hay veces que las fuentes son distintas

sabe que hemos nos hemos referido a los mismos y por eso

cuando nos empezamos a documentar nos quedamos un poco harrituas entonces

ha dicho al final de su bueno ha dicho que es un problema en todos los sitios eso es verdad pero claro a nosotros lo que nos concierne es esto

y en esto tenemos que trabajar no le he dicho en la intervención anterior que

sabemos que la delegación de bizkaia ha empezado a insonorizar

no de una forma sistemáticas sino en algún centro que por lo visto era ya algo muy insoportable

se van a poner en marcha una serie de medidas muy bien luego hay una cosa solamente que me ha dicho que tiene identificadas las medidas correctoras

entonces esperando que interprete esto como un apoyo y no como

razonable que esperamos que pueda ser suscrita por todos los grupos y que va a ser en realidad en apoyo en esa moción le pediremos la realización de sonometrías que yo creo que es algo que ya están empezando hacer no en todos los comedores pero que sistematicemos la lucha contra el ruido

la medición de sonometrías y que hagamos un plan en el tiempo que haga falta porque esto es una cuestión de dinero pero que hagamos un plan

en todos los colegios probablemente de aquellos que lo sufren de forma más grave

y desde luego le tengo que dar la razón la sensibilización que es la parte más difícil porque usted puede poner freno o corregir los defectos arquitectónicos la sensibilización es mucho más difícil pero es igualmente necesaria déjeme que le ponga uno de esos ejemplos

pero que yo creo que son muy clarificadores mire como usted sabe yo vivo en la frontera bueno

con gran alegría vimos los de esa zona que se abrió otro en bayona fuimos

que todo el mundo mencionaba el silencio

de ruido al que estamos acostumbrados es que entras en el de bayona y lo primero que dices es pero aquí no hay gente

es decir la sensibilización es vital tenemos todos que hablar más bajo nos podemos comunicar

igualmente es lo más difícil nosotros por ahora le vamos a pedir pero como apoyo no como crítica sino como apoyo para conseguir un poco de aceleración

y que vayamos implementando medidas las que podemos tomar las físicas para conseguirlo y quizá una recomendación a los profesores de empezar a cultivar la cultura de hablar mucho

se puede reducir el ruido del comedor escolar optando por elemento fono absorbentes

cambiando la vajilla de loza y de cristal por una de policarbonato o incluso

el abordaje de la problemática concreta en los centros se inicia con alguna petición o requerimiento de actuación a la atención de responsable del servicio de prevención el servicio de prevención está en perfecta coordinación con los servicios de obras de dirección e infraestructuras

son frecuentes actuaciones del tipo de acondicionamiento acústico a través del falso techo insonorizaciones y aislamiento acústico de armarios cambio de mobiliario

mesas fijas y bancos que no se mueven vajillas bandejas

este aparato indica el nivel de ruido avisando cuando se superan los límites establecidos

según diferentes niveles aprovecho para comentar que a partir del curso que viene se ha previsto la instalación en nuestros centros de un sistema de semáforos de este tipo que cumplirán una doble misión

como ve vamos en consonancia y ya estamos dando pasos

de acuerdo con la memoria de actividades del pasado curso dos mil dieciséis dos mil diecisiete se realizaron actuaciones en comedores talleres de panadería calderería soldadura gimnasios aulas de instrumentos despachos patios etcétera

eskerrik asko uriarte sailburua zure azalpenagatik eta nolabait justifikatzeko egin duzun ahaleginagatik y sí digo que usted ha hecho un intento de justificación porque a nuestro entender y a los hechos me remito

no es mantenerla en las actuales instalaciones de los años ochenta con muchas deficiencias

se le ceden unas instalaciones en las que el propio gobierno vasco ha invertido uno millón de euros para su rehabilitación tampoco

mientras la futura escuela de diseño privada solamente su ayuntamiento donde va a ser ubicado le ha dotado de quinientos mil euros iniciales y solo para adecuar los espacios del nuevo edificio

de la petición para ampliar su oferta formativa actualmente solo pueda impartir dos de las cuatro especialidades que se pueden impartir tal y como se hace en nuestras comunidades limítrofes y todo porque el departamento no lo impulsa no es apoyar el no habilitar la posibilidad de dar másteres y postgrados y que el alumnado que lo

y tampoco es apostar el no estudiar la posibilidad de abrir una sede en otro territorio más aún cuando en la actualidad el sesenta por ciento del alumnado

y más teniendo su departamento conocimiento de la disposición que hay para ello ejemplo en cataluña hay una escuela la cual tiene siete sedes en el territorio

que no estamos en contra de que haya iniciativas privadas pero que las instituciones de este país hagan una apuesta clarísima hacia estas dándole todas las facilidades en detrimento de las iniciativas públicas

detrás de todo esto hay un modelo determinado un modelo que tiende a la privatización de las enseñanzas superiores

publikoak gasteizkoak bost autobusetan du publizitatea cinco autobuses en gasteiz estos días en toda la comunidad autónoma vasca y gracias a la imaginación de la escuela que con motivo del día ocho de marzo pintó un autobús urbano a cambio de unos días de propaganda para la escuela del departamento cero patatero dos el plazo para realizar la solicitud de admisión

cuándo ha publicado algo y puesto enlaces su departamento para poder realizar dicha solicitud sabe usted cuándo antes de ayer el seis de junio muy significativo proporcional a la apuesta que ustedes

para darle vuelta a esta situación ante la dejadez de su departamento eskerrik asko

asimismo fieles al espíritu innovador y creativo el dos de marzo del presente año se presentó su cambio de nombre e imagen corporativa id arte tanto el nombre como el logo son fruto de un proceso participativo

desde el inicio de su andadura el centro ha multiplicado por cinco el número de alumnos y alumnas pasando a un total de trescientos cuarenta y cinco en el presente curso

además el alto porcentaje de empleabilidad de los distintos estudios nos indica que nos encontramos ante un proyecto educativo totalmente asentado y mirando al futuro los proyectos que hay en la mesa abarcan diversos ámbitos de actuación como la mejora de la oferta desde el punto de vista lingüístico o la ampliación de la oferta académica que sí estamos impulsando

bultzarazten omen du kutxabank partaidetza horiek saltzera kutxabank se tiene que desprender al parecer de sus participaciones industriales y no es una mala opción la de ponerlas en manos o vendérselas a las fundaciones bancarias que son propietarias

está supervisando o verificando su departamento este proceso que tiene que ser un proceso ordenado

el pasado veinte de marzo respondí por escrito a una pregunta que formulaba usted en relación con esta misma cuestión en él

fundaciones no ha recibido comunicación alguna de las fundaciones bancarias existentes en la comunidad autónoma de euskadi en relación con la adquisición de participaciones empresariales de ningún tipo ahora me gustaría añadir en relación con esta respuesta que ya

que con arreglo a la ley de fundaciones aprobada por esta misma cámara hace ahora dos años en junio del año dos mil dieciséis esta comunicación debería producirse a través

salvo que la adquisición de participaciones empresariales significa la adquisición de una participación mayoritaria en una determinada sociedad mercantil la última memoria anual revisada y depositada

la del año dos mil diecisiete se presentará a partir del treinta de junio de este año con arreglo a las previsiones legales por lo que

las auditorías realizadas en el gobierno ponen de manifiesto que no se observan variaciones relevantes en el perímetro de consolidación de este tipo de entidades por tanto vamos a seguir las pautas legales

señor erkoreka evidentemente es el protectorado de fundaciones el ente que tiene que supervisar todo este proceso

sí es cierto que las fundaciones ya han adquirido participaciones industriales

y también la bbk ha anunciado que va a dedicar cien millónes de euros a adquirir participaciones industriales

especialmente importante por un lado está la cuestión de cómo tienen que comunicar esa adquisición de participaciones usted lo ha dicho por escrito tienen que comunicarlo a través de la memoria o dependiendo de

sea en un porcentaje de la sociedad mayor del veinte por ciento tienen que comunicárselo expresamente a través de una declaración responsable pero aparte de esa cuestión que ya

una función por parte del protectorado de fundaciones que es

de los fines fundacionales de las fundaciones en el artículo cuatro de la ley de fundaciones

fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas físicas o jurídicas y que en todo caso los criterios de selección del colectivo de personas beneficiarias entiéndase aquí de personas jurídicas deberán ser

quiere decir esto que cuando las fundaciones bancarias adquieren participaciones industriales lo tienen que hacer de una forma

es decir se tiene que hacer de forma planificada y

entiendo yo entiende nuestro grupo tiene que ser supervisado por

podríamos incurrir en la arbitrariedad y no quiero pensar en que determinadas adquisiciones por parte de las fundaciones pudieran provocar un riesgo de solvencia que como dice usted a día de hoy no se ha materializado pero que podría suceder y que también en ese caso

tanto la vigilancia como la inspección como incluso en su caso la intervención que evidentemente entendemos que este no tiene porqué ser el caso pero sí creemos que

hacer este proceso de forma ordenada de forma planificada es fundamental

hay decenas de empresas que están a día de hoy en manos de kutxabank y que entendemos que las participaciones esas participaciones industriales hay que procurar que sigan en manos vascas que sigan en manos fiables y confiables y que no suceda que de alguna manera kutxabank se vaya desprendiendo de participaciones sin que sea un proceso

de manera que sea un proceso digamos a espaldas de la ciudadanía vasca a espaldas de este país porque la propia ley dice que tiene que ser un proceso transparente y organizado

señor becerra como le he dicho en la primera parte de mi intervención

que estas vayan a abordar también las fundaciones bancarias y también por supuesto

su adquisición de participaciones en entidades empresariales todo esto lógicamente lo hará en coherencia con

atribuciones en materia de control de entidades de carácter financiero y por supuesto también en sintonía con lo que al propósito pueda determinar el departamento de desarrollo económico ahora bien

un tribunal de la inquisición es un órgano lo prescribe así claramente la exposición de motivos de la ley aprobada por la cámara

de vigilancia y de inspección pero una inspección que está acotada y circunscrita a unos términos muy concretos por lo que respecta concretamente a la

hay un artículo el cincuenta y tres de la ley que dice que se llevara a cabo cuando exista constancia o indicios claros de un incumplimiento de las obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico por parte de la entidad correspondiente o

ni hay motivos para pensar que existen indicios ni tampoco motivos para existir para considerar que haya un incumplimiento objetivo de estas obligaciones legales por tanto lo normal lo lógico lo razonable es en principio por parte del protectorado de fundaciones esperar a que se

de las fundaciones bancarias la memoria anual que corresponde realizar en este caso en relación con el ejercicio dos mil diecisiete y a partir de ahí empezar a hacer a llevar a cabo los análisis de los estados financieros que puedan efectivamente empezar a conocer con profundidad que es lo que las entidades bancarias están haciendo a propósito de su participación en empresas industriales

de asesoramiento pero no el tribunal de la inquisición eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako

eskerrik asko mahai buru andrea egun on denoi señor erkoreka le preguntamos hoy en relación a la actuación de su departamento ante aquellas empresas

a mí como parlamentaria y a nuestro grupo elkarrekin podemos nos parece muy grave que con dinero público de por medio se estén vulnerando los derechos de huelga

se despida ilegalmente a trabajadoras se las mantenga en fraude de ley como falsas autónomas

o se incumplan normas de seguridad y salud laboral por eso le preguntamos

cometidas por empresas en el marco de las contrataciones públicas mila esker eskerrik asko garcía andrea erantzuteko

señora garcía yo comparto plenamente con usted y con su grupo la preocupación por la posible existencia de vulneraciones de la legislación laboral no solamente por parte de las empresas que estén contratadas por la administración pública sino también con las empresas que operan en el mercado independientemente de que gocen o no de alguna contrata pública lo que ocurre es que

adolece de quizás un defecto en el enfoque no porque la ley aprobada por esta cámara en abril del año dos mil dieciséis en relación con las cláusulas sociales de la contratación a propósito del órgano responsable para velar por el efectivo cumplimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública es que el órgano responsable es el órgano de contratación siempre el órgano de contratación así lo dice la ley insisto aprobada por esta cámara a través de los mecanismos contractuales

en este sentido las cláusulas sociales son exactamente igual que el resto de las cláusulas de la contratación administrativa no tiene un tratamiento diferenciado ni singularizado y el departamento de gobernanza no es tampoco en este caso una suerte de fiscalía general que pueda suplantar a los órganos de contratación en una labor que les encomienda expresamente la ley

un sometimiento de los órganos de contratación a vigilancia permanente el servicio jurídico central que depende del departamento de gobernanza interviene en dos tipos de ocasiones en dos primero cuando un órgano de contratación somete alguna cuestión controvertida jurídicamente a un dictamen jurídico

cuando la relación contractual deviene conflictiva y dos interviene en los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa entonces sí la representación del gobierno corresponde al departamento de gobernanza

no estamos legalmente habilitados para establecer protocolo alguno en este sentido compartiendo insisto como comparto con usted la preocupación por la posible existencia de vulneraciones de la legislación laboral no solamente por parte de las empresas contratadas por la administración sino también por las empresas que no la están eskerrik asko

señor erkoreka usted como yo también todas las personas que nos están escuchando saben que en euskadi hay empresas subcontratadas por el gobierno vasco y otras administraciones forales o municipales que están siendo condenadas por vulnerar derechos laborales

como ya me ha manifestado pero por eso le pregunto qué está haciendo al respecto y si cree que hay algo que hacer señor erkoreka por su respuesta

hayan tenido hasta hoy ningún interés por hacer defender los derechos de las personas trabajadoras que hayan tenido ningún interés en estudiar cambios legislativos ni en interponer acciones legales en aquellos casos en los que se están vulnerando las leyes laborales o administrativas tampoco se han preocupado de colaborar con aquellos departamentos competentes como el departamento de trabajo y justicia pero le recuerdo alguna de estas conductas empresariales que le he citado además de sancionables administrativamente también pueden ser delitos contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores

último de esta situación desde elkarrekin podemos creemos que si hay voluntad política se pueden defender los derechos de las personas que trabajan para las administraciones públicas

y también sus derechos sindicales quienes son responsables de ello como usted deben encontrar las fórmulas para hacerlo nosotras las tenemos claras y esperamos que usted también las tenga le voy a poner varios ejemplos donde parece que usted y su gobierno del que es portavoz están mirando para otro lado el museo

y el propio museo han recibido ya dos sentencias de nulidad de despido por vulneración del derecho de huelga de las educadoras subcontratadas y a pagar seis mil doscientos cincuenta euros de indemnización por cada una vendrán más y sin embargo su gobierno

en una instrucción que vulnera derechos fundamentales no lo podemos comprender

este grupo de entidades tiene una larga tradición de trabajo con las administraciones vascas entre ellas con el gobierno vasco pero en los últimos años también ha desarrollado una larga tradición de vulneración de derechos laborales despidos nulos de sindicalistas vulneración de negociación colectiva o vulneración del derecho de huelga y ahí siguen

y sentencias por servicios mínimos abusivos en las huelgas y empresas subcontratadas por la administración limpieza en osakidetza y otros departamentos del gobierno vasco la empresa garibaldi también tiene en su haber

entre otras vulneraciones y ahí la tenemos ganando concursos públicos convocados por su gobierno a otras empresas que cumplen con todas sus obligaciones legales

en las que ha participado su gobierno u otras administraciones de euskadi y en las cuales alguna responsabilidad tienen las empresas empleadoras y por extensión ustedes por no poner mecanismos para evitar

que la noticia fuera que su gobierno defiende con todos los instrumentos de los que dispone a trabajadoras y sindicatos que las defienden que la noticia fuera que existe un cambio de actitud de su gobierno ante el desprecio ninguneo y oposición
ante cualquier forma de sindicalismo y defensa de los derecho laborales eskerrik asko eskerrik asko garcía anderea bukatu zaizu denbora erkoreka jauna zurea da hitza

con un mensaje perfectamente elaborado con independencia de lo que yo le fuera a responder porque

de que el gobierno no está haciendo nada en relación con el control de las cláusulas sociales de las empresas contratadas en absoluto

con invocación expresa de la norma aprobada por esta cámara en del año dos mil dieciséis por tanto de mi respuesta no puede extraer usted esa conclusión después

de la legislación laboral pero me cita supuestos en los que el gobierno vasco no tiene ninguna implicación contractual ninguna me habla de otras administraciones públicas como si este departamento el que yo dirijo tuviera alguna responsabilidad global o universal en relación con todas las contrataciones

respecto a lo que hacen las administraciones en euskadi pero insisto que en fin de mi respuesta desde luego esa conclusión no se puede traer

hay algo que se puede hacer sí se puede hacer cuando usted tiene conocimiento de que alguna empresa contratada por la administración incumple cláusulas sociales tiene muchas salidas

significa incumplimiento de la legislación laboral tiene los mecanismos de la inspección de trabajo y de las acciones legales correspondientes pero es que además caben

una vulneración de las cláusulas sociales de la contratación pública y hay el recurso contra el propio órgano de contratación el propio órgano de contratación que es el que ley habilita para

además hay más instancias en el gobierno que puede recibir consultar y emitir

gracias señora presidenta lehendakari miembros del gobierno señorías buenos días a todos señora artolazabal usted decidió iniciar un procedimiento de reforma y modificación de lanbide

ni necesario ni oportunamente político y por eso no lo hicieron cuando usted vio la potencialidad que tenía lanbide lo que realmente estaba haciendo y lo que necesitaba el gobierno vasco como instrumento pues decidió iniciar esta reforma le tendimos la mano y en esa

y se nos dijo que se estaban iniciando una serie de experiencias piloto en determinadas oficinas fundamentalmente para ver qué efecto tenían sobre lo que era

de los medios con los que se contaba en esas oficinas y la reforma del personal y las funciones del personal que trabaja en lanbide de cara a conseguir los objetivos que plantean

lo que quiero conocer es si efectivamente las experiencias piloto han terminado de alguna manera si los efectos se han trasladado y qué opinión tiene de quienes han llevado a cabo esas reformas piloto sobre el fondo
y los instrumentos con los que usted pretende hacer la modificación o reforma de lanbide muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

señor ruiz de arbulo usted conoce la reforma que nosotros le hemos presentado también sabe que todos los cambios y todos los procesos de mejora que se presentan llevan una serie de novedades y de modificaciones que generan

en las organizaciones que se van a implantar y que por tanto es algo natural que esas situaciones

hemos estado trabajando como usted bien ha dicho de una forma coordinada con los diferentes grupos también de la cámara para contar con la opinión

y en el consejo de administración de lanbide en el que participan agentes empresariales y sindicales se ha trabajado en este proyecto de reforma y también como usted ha

con una mayor calidad si cabe de lo que se estaba haciendo tanto para las personas usuarias como para las personas profesionales de lanbide y este es uno de los objetivos prioritarios que tiene este gobierno

para analizar y definir un modelo homogéneo actualizado

en el dos mil quince se continua trabajando en este modelo para llevar a adelante una prestación

mejorando en su orientación en su formación y asistencia y como conclusión en el año dieciocho hemos presentado la reforma en el caso de la reforma de lanbide

ese modelo nuevo de atención a los usuarios ese modelo nuevo de organización de las oficinas de forma paulatina inicialmente el objetivo que yo como consejera tenía era a las treinta y tres oficinas dado que trabajo coordinado y participativo con los responsables de las oficinas se me pidió que se

hiciera de otra forma así lo hice y se trasladó la puesta en marcha de este nuevo modelo a dieciséis oficinas para ello lo que hemos hecho

al objetivo que la reforma tiene entonces en este momento se va a trabajar con esas dieciséis oficinas menos de diez trabajadores lo que me he comprometido es a llevar a cabo la evaluación en otoño de este año incorporar las mejoras que veamos y además también sometido a lo que
este pleno y esta cámara estime oportuno en el pleno monográfico en el que se va a debatir esta reforma mila esker eskerrik asko

señora artolazabal no he entendido bien su respuesta el proceso mental que yo tenía era que se hacía una experiencia piloto se valoraba y luego se proponía la reforma a la cámara o se nos consultaba cuál era nuestra opinión sobre esa reforma

resultados a la hora de elaborar un documento de trabajo que es con el que se va a hacer la reforma definitiva no entiendo para qué se hace esa experiencia piloto

con el que se va a poner en marcha la reforma si no se han evaluado las experiencias piloto anteriores y no conocemos la opinión de quienes las han llevado a cabo difícilmente podemos saber qué impacto directo tienen de las personas que conocen realmente el servicio y no podemos implantar ningún tipo de mejora en el documento si resulta que no conocemos el resultado de esas experiencias yo le vuelvo a preguntar

se ha evaluado la experiencia piloto de las primeras oficinas se conoce está documentado cuál es la opinión de los técnicos que lo han hecho de los responsables de las oficinas qué opinión tienen los responsables de las oficinas de lanbide de esta reforma

nuestra labor como parlamentarios para tratar de que

usted no tiene conocimiento ni de cuál es la opinión ni de cuál es la marcha de esas experiencias piloto muchas gracias eskerrik asko

señor ruiz de arbulo me he debido explicar fatal yo le he explicado o le

una planificación que emana desde el año dos mil catorce que se ha ido

dicho modelo que ha contado con la participación de más de cincuenta agentes que se ha llevado a cabo un trabajo por parte del departamento junto con el consejo de administración para llevar a cabo esa reforma de lanbide que es la que se ha presentado en esta cámara para su debate se ha implantado y se está implantando en dieciséis oficinas y yo siempre he dicho que este análisis y esta evaluación se iba a llevar a lo largo del otoño de este año dos mil dieciocho que durante

esta experiencia piloto se obtendrían las mejoras que se emanarían de lo que es el trabajo ordinario y se incorporarían junto con lo que emane de esta cámara en lo que es el monográfico de empleo yo siempre he dicho eso señor

se reunió con diferentes responsables y les dijo quiero una ope limpia el que hace dicha afirmación

porque sabe que hasta ahora las ope no han sido lo suficientemente limpias y porque conoce el funcionamiento de osakidetza me equivoco

pues me he sentido como una pringada me he sentido como una pringada

y ahora todo el mundo dice que es vox populi que todo el mundo lo sabía que si es habitual que si ha sucedido todo los años etcétera entonces

por qué por qué nadie ha metido mano para poner fin a este todo despropósito a este fraude por qué se mantiene esa impunidad por qué después de pasar filtros y filtros muy exigentes

se tiene que pasar por el aro para conseguir una plaza fija pasar por el aro para optar a una plaza fija

cómo está organizado osakidetza para imposibilitar este tipo de actuaciones

mire señor darpón con independencia que se vaya por la vía judicial

aunque se depuren las responsabilidades que hay que depurar las responsabilidades

si no se cambia el modelo de contratación de gestión de listas todo lo que le acabo de comentar anteriormente

impunidad no va a ver ope limpias y usted lo sabe usted lo sabe

paciente de cincuenta y seis años que acude a la consulta con un cuadro de tres años

en relación con la micción urinaria con signos de urgencia miccional

obesidad e hipertensión arterial no hallazgos de infección en ningún examen se plantea dentro del diagnóstico diferencial la posibilidad

uno criterios diagnósticos de inclusión y mínimo tres exclusiones para la cistitis intersticial dos describe el test de sensibilidad al potasio para el diagnóstico de la

y en qué se fundamenta así con esa misma cara que usted pone y la que ponen todos los asistentes se quedaron los casi doscientos opositores y opositoras de las prueba de anestesia y

acudían dopados y dopadas a la prueba obviamente estamos hablando de un caso el número cuatro

y sin embargo aparecía en la prueba de anestesia las personas opositoras que obtuvieron más de noventa puntos en esta prueba fueron treinta y nueve

todas ellas que tuvieron que contestar adecuadamente a este caso para obtener una alta puntuación es lógico pensar que estas treinta y nueve personas no son urólogos es una ope de anestesia a estas treinta y nueve personas se les había pasado el sobre además de esta

con el mismo patrón algunas han sido paralizadas angiología y cirugía vascular anestesia cardiología y cirugía plástica

el lunes usted nos decía que no tenía pruebas para paralizar ninguna ope las tiene ahora nosotros no hemos hecho más que escuchar a médicos especialistas de los hospitales de osakidetza que nos explicaron que en sus hospitales

estaban repartiendo sobres repito repartiendo sobres con las preguntas de sus exámenes a sus compañeros y compañeras de servicio

es verdad es una práctica habitual

les dicen con qué frase iniciar la prueba práctica y que palabra subrayar para que sean identificables

nos dieron los nombres de quienes iban a superar ampliamente las pruebas registramos dichos nombres ante notario mediante un acta de manifestaciones y sucedió acertamos aquí tiene el acta si si ahora se la daré señor darpón de verdad no le parecía prueba suficiente este acta el lunes

ya han presentado denuncias en fiscalía siguiendo su recomendación por cierto el ararteko ha actuado de oficio miembros de algunos tribunales de los exámenes de médicos especialistas se han sumado a las críticas públicas de los fraudes de exámenes de osakidetza tenemos que decir aunque inicialmente notamos cierta reticencia de la dirección general de osakidetza

no sabemos si porque de verdad le preocupa o porque ha saltado a los medios pero ha abierto varios expedientes administrativos porque lo que se pone en marcha esos procesos de investigación

las ope de las diferentes pruebas de médicos especialistas siete concretamente que están bajo sospecha deben ser paralizadas investigadas y suspendidas de forma cautelar mientras el

pero nosotras insistimos en que no son todas las ope solo deben ser paralizadas las de especialidad médica creemos que hay que respetar a los más de mil miembros de los distintos tribunales de las ope dos mil dieciocho

que en este momento ya se han examinado o están en proceso de ello pero las pruebas bajo sospecha que afectan a varios cientos de médicos especialistas repito médicos especialistas deben investigarse y suspenderse es una buena oportunidad

para analizar y debatir en serio carencias de transparencia y democracia de nuestros hospitales en las osi

de compartir decisiones la cultura democrática aún no ha llegado a algunos espacios de los hospitales ambulatorios y centros de salud es la ética

muchos jefes de servicio tienen que abandonar esa actitud de verdaderos reyes de taifas en sus servicios reyes de taifas que favorecen el reparto

y desarrollando culturas donde la crítica está mal vista

para progresar como profesionales sabemos que las personas más indignadas son los jefes y jefas de servicio honradas y éticas que son

del buen hacer científico y de las consultas unidades de hospitalización y quirófanos no todo el mundo participa de la corrupción clientelar detectada en osakidetza señor darpón

lo hayan consentido o hayan colaborado con el proceso de filtración de exámenes pero no son todos ni todas

tenemos una cuenta pendiente con todas aquellas personas que estudiaron para alguna

y no tuvieron ninguna oportunidad ninguna oportunidad porque no han tenido garantizado el derecho básico

la igualdad de oportunidades le repito señor darpón la igualdad de oportunidades

ha ocasionado a nuestro sistema público de salud una perdida continuada de profesionales

y seguramente encontrando oportunidad en el sector privado

señor consejero tiene el departamento de salud tomada alguna decisión para acabar
con la filtración de exámenes de las ope de osakidetza besterik ez eskerrik asko

como todos ustedes saben esta no es ni la primera ope de osakidetza

señora ubera y señora macazaga la última que vamos a convocar de hecho osakidetza se caracteriza por ser una de las administraciones públicas tanto de euskadi como del estado

concretamente desde mil novecientos noventa y cinco ocho las ope convocadas porque nosotros estamos a favor del empleo público y usted también debiera estarlo para entender la complejidad del proceso de una oferta pública de empleo en osakidetza considero conveniente explicar todo el proceso

y la minuciosa labor llevada a cabo con el fin de garantizar señora macazaga la transparencia y la igualdad de oportunidades para todas las personas inscritas como decía previamente estamos ante una de las ope más voluminosas de la historia de euskadi

de ochenta y seis categorías profesionales diferentes

un veinte por ciento no residentes en euskadi las cifras reflejan por sí solas

en total han sido constituidos ochenta y seis tribunales órganos colegiados independientes y soberanos en los que participan mil trescientos setenta y seis profesionales de osakidetza

y el buen desarrollo de los exámenes personas que son profesionales funcionarios de la administración pública y que no merecen de ningún modo

se ponga en cuestión los tribunales están compuestos por ocho personas un presidente o presidenta normalmente un director o subdirector de una de las organizaciones

nombrado a través de concurso público no un cargo político constituye como secretario un técnico de la administración generalmente de perfil jurídico

que las personas que opositan y uno de los vocales

a propuesta de los sindicatos firmantes de la oferta pública de empleo en cada uno de los tribunales que usted parece que sin argumentos cuestiona no participa en los tribunales ningún alto cargo ni del departamento de salud ni de la dirección general de osakidetza ni del ivap y créame señora macazaga

no se ría usted tanto es una cosa muy seria con el fin de ofrecer las necesidades garantías de integridad confidencialidad rigor equidad y transparencia en esta ope se han tomado además nuevas medidas

me gustaría resaltar las siguientes por primera vez los tribunales son paritarios porque somos muy conscientes de que los jefes de servicio por edad

han entrado muchas personas en todos esos tribunales que nunca habían estado en ninguna de las ope previas además también por primera vez

se ha establecido que la primera prueba de todas las categorías no la pongan los tribunales y ha sido

fruto del preacuerdo de la mesa sectorial de sanidad de junio del dos mil diecisiete luego acordado con los sindicatos

con acuerdo con los sindicatos y se puso para garantizar mejor el proceso

y sabe perfectamente cuáles son sus responsabilidades también se ha establecido un protocolo de seguridad que recoge entre otras medidas la custodia de la prueba en una sala de seguridad

horas antes de la celebración de la prueba los exámenes

dos horas antes de su realización y en el propio local donde se realizaban los exámenes recordando a todos los miembros de los tribunales

y que son los últimos responsables de la idoneidad y transparencia del proceso en cuanto a la corrección de las primeras pruebas se ha llevado a cabo mediante un sistema automatizado de lectura que garantiza

la inmediatez y la total transparencia del proceso y finalizada la prueba se ha procedido a la publicación de las preguntas del examen y las plantillas de respuesta para que cada opositor que se ha quedado en posesión de una copia de su examen pueda llevar a cabo una autoevaluación

y por primera vez este ejercicio que no ha sido puesto por los tribunales vale el sesenta y cinco por ciento de la nota total el sesenta y cinco por ciento de la nota total

donde por la especificidad de la práctica clínica además de la prueba teórica existe una prueba práctica

y se hace en todos los servicios de salud del estado y en muchos de fuera del estado esta última prueba

y ha sido elaborada por el tribunal calificador o por quien este ha determinado

generalmente de casos clínicos es destacable que a pesar de la magnitud de la ope y más de diez mil personas examinadas solo se han recibido

cincuenta y ocho quejas todas referentes a preguntas concretas formuladas en las primeras pruebas los exámenes teóricos

no obstante y como somos los primeros interesados y responsables de velar por la objetividad la transparencia y la adecuación de las pruebas planteadas a fin de garantizar la igualdad de oportunidades ha sido

en reunión celebrada el lunes cuatro de junio el que ha encargado un análisis exhaustivo e independiente de coherencia de los resultados

de las sesenta y siete realizadas y de las que faltan por realizar de las especialistas hospitalarios de las especialistas de atención primaria y del conjunto de las pruebas de la ope porque nosotros no vamos a extender un manto de prejuicio además

ha abierto expedientes informativos de forma secuencial cuando ha tenido indicios y ha considerado que era pertinente a fecha de hoy son cuatro las categorías que están siendo investigadas

las acciones administrativas de estas especialidades se han paralizado preventivamente y no tenemos ningún elemento de

el resto no obstante se van a analizar todas las categorías

de coherencia encargado se procederá no vamos a dejar de hacer nada que consideremos

de falta de transparencia en cualquiera de los pasos realizados nada la actual ope de osakidetza pretende dar estabilidad al noventa y cinco por ciento de la plantilla

muy seria ahora bien tampoco vamos a tolerar acusaciones sin fundamento

en la que tanto miles de personas han puesto sus esperanzas y puede estar usted segura y la señora ubera también de que vamos a responder con rotundidad tanto a las falsedades como a las irregularidades si se demuestran

con las debidas garantías y le puedo asegurar que nadie tiene más interés que nosotros en que esta oferta pública de empleo se desarrolle con total transparencia y equidad

señora ubera entiendo que usted otorgue credibilidad a los informes que han realizado determinados sindicatos créame que lo entiendo

suposiciones o sospechas no dude de que estamos actuado con celeridad y diligencia

lo vamos a seguir haciendo compartimos con usted que el proceso necesita aclaración por el conjunto de los opositores y por el buen nombre del sistema público de salud no nos va a temblar la mano sea quien fuere si se demuestra alguna irregularidad

y eso es precisamente lo que estamos haciendo y a lo que nos hemos comprometido inork irregulartasunak

remitió el citado escrito de manera inmediata al tribunal correspondiente instando la celebración de una sesión extraordinaria la sesión se celebró el viernes uno de junio con el objeto de analizar el contenido del escrito presentado y la idoneidad de las pruebas efectuadas ante la posible existencia de una duda razonable sobre el transcurso del proceso osakidetza el primero de los expedientes informativos de los que hoy les hemos dado cuenta pero créame voy a actuar desde la prudencia

ante una oferta pública de empleo en la que aún quedan pendientes la realización de los exámenes de diferentes categorías supongo que compartirán conmigo que no es justo ni oportuno paralizar una oferta pública de empleo que afecta a miles y miles de personas una oferta pública de empleo en la que faltan los exámenes

personas ayer se celebró una reunión de la comisión de seguimiento de la ope comisión en la que participan

y los sindicatos los sindicatos firmantes de la oferta pública de empleo tanto

coincidieron en la necesidad de dar continuidad a la realización de los exámenes de las categorías pendientes de acuerdo

calendario porque no objetivaron para las pruebas pendientes ningún riesgo de incidencias señora macazaga y señora ubera

lo dijo ayer la comisión de seguimiento de la oferta pública de empleo con

y los sindicatos firmantes porque nosotros también sabemos hablar con los profesionales y los sindicatos beraz

rigor y respeto respeto no hacia el consejero que es lo mismo está ya

hacia los y las profesionales que participan en el desarrollo de la actual ope los que están en los tribunales

personas perfectamente capacitadas y honradas en tanto en cuanto nadie demuestre lo contrario a los cuales aprovecho para agradecer su labor y profesionalidad

guk ez ditugu beraien independentzia profesionaltasuna eta burujabetza zalantzan jartzen usted misma señora macazaga en su comparecencia del lunes ante los

afirmaba que no cuestionaba la actuación de los tribunales y de sus profesionales qué cuestionaba entonces cuando las únicas sospechas expuestas son de filtración de los exámenes y estos han sido confeccionados y corregidos exclusivamente por expertos contratados por el ivap bajo cláusulas de confidencialidad y miembros de los tribunales por lo tanto sin intervención alguna

dónde ve usted el enchufismo político nosotros vamos a continuar actuando con responsabilidad y transparencia que es la responsabilidad

y es también lo que solicitamos al resto de agentes organizaciones sindicales y grupos políticos solicitamos que el resto de agentes actúen con la misma responsabilidad

se nos exige no quiero dejar de transmitir mi máximo respeto y enviar un mensaje de tranquilidad

de la oferta pública de empleo desde aquí les garantizo que todo el proceso se seguirá desarrollando tal y como estaba previsto además de las

de forma transparente con el ararteko y con la fiscalía si así lo estiman eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna ubera andrea zurea da hitza

no habéis demostrado ni interés ni sensatez ni prudencia

no sospechó de todos los tribunales que el ivap

hay dos ope de dos especialidades que hay evidencias claras también

con especialistas propios y tiene que recurrir a osakidetza para el diseño del examen o a otros profesionales no dudamos

pero algo sucede antes de que el examen sea custodiado no le parece señor consejero

personas que pagaron unas tasas una preparación incluso se desplazaron como usted ha dicho un veinte por ciento

mire señor darpón creo que no me ha escuchado bien o

discurso que usted traía hecho las ope del aparato digestivo

que también están bajo sospecha deben ser

investigadas y suspendidas de forma cautelar mientras el organismo externo insistimos que ha contratado analiza cada una de esas ope

décimos que no son todas las ope solo deben ser paralizadas las de medicina especialista creemos que hay que respetar efectivamente

con usted hay que respetar a todos los miembros de distintos tribunales de la ope dos mil dieciocho estamos de acuerdo

como a las personas opositoras también estamos de acuerdo y por eso creo que debemos una responsabilidad que usted no está teniendo hay que conseguir instalar señor darpón como le decía la cultura de compartir decisiones y democracia en aquellos ámbitos de osakidetza que aún no ha llegado no deje que su sistema público de salud parezca un queso gruyer

y todas y sobre todo tenemos y tiene una cuenta pendiente con todas aquellas personas víctimas

las de especialistas que no tuvieron ninguna oportunidad porque no se les garantizó un derecho básico señor darpón el de igualdad de oportunidades

nos preocupa también la pérdida de talentos porque esta práctica histórica de corrupción

público de salud una pérdida continuada de profesionales

aparte de investigar qué va a hacer su departamento para que esta práctica clientelar a mi modo de ver no vuelva a ocurrir

le dejo el acta para que no cuente solo con sospechas y ahora tenga también pruebas mila esker eskerrik asko macazaga andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

tres mil trescientos treinta y cinco plazas ochenta y seis categorías

objetivo estabilidad para el noventa y cinco por ciento de la plantilla

porque son los que verdaderamente hay detrás de esta ope

en consecuencia considero necesario que todos actuemos desde la responsabilidad cada uno de nosotros desde la que nos corresponde yo no tenga ninguna duda desde la mía por nuestra parte estamos haciendo y vamos a hacer todo absolutamente todo

en manos del departamento y de osakidetza para garantizar la transparencia

del proceso como hemos intentado hacer en esta oferta pública de empleo

institucional y somos los primeros interesados en que esta ope transcurra con total garantía y transparencia ahora señores de elkarrekin podemos son ustedes un gran ejemplo de comportamiento ético de la nueva política su secretario general el señor lander martínez sospecha que se va a cometer un delito

hace una quiniela y si fallo me callo y me olvido y si acierto en vez de tratar de evitar sus consecuencias intento sacar redito político y un documento que está registrado antes de la celebración de la ope

señores de elkarrekin podemos de lo único que hay una prueba es de lo que ustedes me acaban de dar que está registrado antes de la oferta pública de empleo con una absoluta falta total de ética porque si se ha producido alguna irregularidad ustedes estaban en manos de haberlo intentado evitar etika baloreak eta erantzukizuna beste guztiaren gainetik egon behar dira por cierto estén ustedes seguros

en cualquiera de las especialidades los profesionales conocen la capacitación de sus compañeros yo mismo a lo largo de mi vida universitaria curso tras curso he comprobado cómo fueron las mismas personas las que habitualmente sacaban las matrículas y las mismas

sería terriblemente injusto verter la sospecha de que los profesionales mejor preparados y más brillantes sacan las plazas por medios espurios desde luego yo ni lo comparto ni lo creo y he tenido
hartas pruebas a lo largo de mi vida profesional isiltasuna mesedez ahora bien

actuaremos con absoluta rotundidad en el supuesto caso que se demuestre cualquier irregularidad por mínima que fuera

señora macazaga qué han hecho ustedes en beneficio de la transparencia y el buen desarrollo de esta ope nada

populista y mediática y juegan con el prestigio de los servicios públicos y ahora también con el empleo de las personas ustedes han hecho públicamente

correspondiente a la estructura del sistema sanitario soy yo no lo han remitido para la comprobación de esos nombres que dicen que tiene tampoco lo han llevado a la fiscalía

y solo lo han llevado a la prensa señora macazaga a la prensa

si el señor lander martínez tuvo constancia antes de la celebración de las pruebas de que se iba a cometer una irregularidad o un delito estuvo a tiempo de evitarlo habiendo puesto la información

o trabajar por la igualdad de oportunidades su objetivo era desprestigiar al sistema público de salud

y eso es muy grave además de lamentable considero sinceramente que como representantes públicos han cometido ustedes una verdadera irresponsabilidad

arduraz eta erantzukizunez jarduten dugu nosotros tenemos por costumbre actuar con rigor y prudencia así hemos venido trabajando hasta ahora y así lo continuaremos haciendo

ha puesto y va a continuar poniendo todas las medidas a su alcance para que esta ope una de la más importante y también más compleja por su volumen se lleven a cabo con garantías de transparencia

entre sus opositores quiero suponer señora macazaga que conoce usted la última convocatoria pública de empleo desarrollada

forman parte del gobierno estoy seguro de que los responsables políticos del sistema de castilla la mancha de salud trataron de actuar con las mismas garantías que osakidetza sin embargo suspendieron

y luego los médicos de familia son tan especialistas como los demás hacen una especialidad mir que se llama medicina familiar y comunitaria en el sistema público de salud hay

en atención primaria y especialistas hospitalarios en fin y créame

de las buenas intenciones ni de las medidas adoptadas para el buen transcurso

sobre el tipo de acusaciones que realizan porque estoy seguro que lo intentaron hacer muy bien

nosotros también a ustedes señores de eh bildu les pido colaboración y responsabilidad me ha preguntado si voy a cambiar el sistema y creo que no me ha escuchado en la primera intervención esta ope tiene completamente diferentes que las ope anteriores precisamente no por sospechar de nadie pero para intentar cada vez garantizar mejor el acceso a todas las personas le repito lo mismo el que tenga alguna prueba que la ponga

la investigaremos de la investigación y de las medidas tomadas que son paralización de las ofertas pública de empleo en aquellos tribunales que hay algún indicio con algo de fundamento

donde no tenemos duda de la honradez de sus miembros y donde no hay ninguna prueba fehaciente

de sus miembros y del ejercicio una prueba tipo test da una curva bimodal pero una prueba tipo casos clínicos

cualquier estadístico esperaremos al análisis estadístico de quien hemos encargado que es un experto independiente

continuaremos trabajando para garantizar la equidad si surgen nuevos indicios en cualquier categoría la suspenderemos temporalmente no tenga usted

en tanto en cuanto no se aclare ayer mismo dirigí yo al ararteko la oferta para que nombre una persona de su confianza técnico del ararteko como observador en los expedientes abiertos por osakidetza porque no tenemos nada que ocultar

si la fiscalía entiende nosotros colaboraremos plenamente

tenga los mejores profesionales que continúe prestando una atención de calidad y que no se viertan infundios que luego

eskerrik asko y como no tenemos ninguna duda de que esto finalizará aquí no se preocupen que veré con ustedes los resultados de todos los procedimientos con muchísimo gusto

es el caso clínico que ha puesto no sé de qué especialidad porque yo en este momento ya no me dedico a eso y a mí no necesito que me aplaudan

nuestro trabajo como organización política y como coalición es hacer

denuncias políticas y denuncias públicas de lo que está sucediendo

hemos hecho lo que hemos hecho y si alguien hoy aquí está desprestigiando el sistema público de salud permitiendo que debajo de su manto suceda esto y permitiendo que la igualdad de oportunidades en el sistema vasco de salud y permitiendo que haya un

que hace que estos doctores el mejor talento que tenemos en el sistema público de salud
se vaya a la sanidad privada martínez jauna así se desprestigia la sanidad pública txaloak martínez jauna

el ocho de junio un documento notarial

de especialidades médicas de la oferta pública de empleo en curso eskerrik asko

lehendakari jauna compañeros y compañeras parlamentarios una pregunta rápida

al comprobar que un tema básico del plan de salud y un tema básico del pacto de gobierno pnv psoe que tiene que ver el trabajo

para intentar amortiguar las desigualdades de salud en nuestro país tenía escasamente

euros de presupuesto con esto se puede monitorear las desigualdades de salud señor consejero eskerrik asko

con la seriedad que creo que le caracteriza no acabo de entender cómo me pregunta

para la lucha contra las desigualdades en salud así que espero sinceramente que la pregunta sea retórica en cualquier caso la respuesta es clara no señor uria

me parecen totalmente insuficientes para luchar contra las desigualdades en salud sin embargo son suficientes para las necesidades específicas

de un trabajo de monitorización de esas necesidades de salud eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza

efectivamente nosotros cuando hacemos esta pregunta nos referimos a la poca prioridad que tiene

por parte de nuestros diligentes políticos más humildad porque hay mucha tarea por delante y más capacidad de consenso al menos en el acceso a la enseñanza pública vasca

el eje vertebrador de nuestro plan y es el eje vertebrador de las políticas

que son diferencias sistemáticas evitables e injustas en la población vasca por cuestiones de género de clase social de lugar de residencia de país de origen o de discapacidad

con la distribución de salud entre sus grupos sociales no puede ser que el monitoreo

sean el elemento central de lo que está usted haciendo en el control

y en el estudio e investigación de las desigualdades de salud en la población vasca

distintos niveles de cáncer de pulmón distintos niveles de esperanza de vida entre grupos de población vasca

de diabetes de bajo peso al nacer y diferencia de acceso a los servicios de salud prevención de cáncer de mama padi etcétera esas diferencias entre nosotros

los pobres se mueren más tienen más enfermedades tienen menos calidad de vida

y sabemos quiénes son los y las pobres en la sociedad vasca sabemos que la pobreza infantil está en el nueve por ciento

vascos y vascas tienen un nivel de pobreza casi extrema siete por ciento aproximadamente

la accesibilidad a los servicios y se intenta desde el gobierno vasco que no se profundicen

y ahora se está amortiguando la brecha de las desigualdades de salud no ha mejorado

los determinantes sociales de salud son más importantes es una cuestión de voluntad política establecer políticas multisectoriales e implantar estrategias de

estas estrategias de promoción de salud necesitan adecuar presupuestos para las actividades que se programan no es suficiente ocho mil euros es la salud pública lo que debe estar en el puesto de mando de su gestión

las desigualdades que es fundamental y también la monitorización que es necesaria que es para lo que es

sabe que comparto con usted la importancia de las desigualdades en salud en una sociedad como la nuestra sabe también perfectamente el esfuerzo el trabajo y las partidas presupuestarias en el conjunto de osakidetza y del departamento de salud que

es una pena que me haya hecho usted hoy esta pregunta que es una pregunta muy importante cuando hoy el tema estaba en otro lado y nadie le va a prestar atención a esto pero en cualquier caso

entendemos el derecho a la protección de la salud como un derecho humano

y lo ejercitamos en euskadi y no como una consecuencia del lugar de nacimiento de la procedencia o de la cotización a la seguridad social de cada una de las personas por ello defendemos la universalidad del derecho a la salud

el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres como uno de los principios que sustentan nuestro sistema sanitario nuestra principal prioridad tanto la legislatura anterior como esta es

y mantenerlo como universal como público y como de calidad pero no por sectarismo ideológico por plena convicción

y quien dirige los servicios de salud estamos realizando intervenciones sobre desigualdades en diversos ámbitos que usted conoce pero destacaría

antes de fin de mes este cribado se realiza de forma oportunista en la actualidad pero sabemos que las mujeres con menor nivel socio económico y educativo

por eso lo vamos hacer poblacional la elección de profesionales en el ámbito de atención primaria que esperamos permita reforzar la educación sanitaria

pese a las trabas que el partido popular nos ha puesto desde el año dos mil doce

de salud y su labor programas de empoderamiento de pacientes nuestras actuaciones sobre las listas de espera la coordinación sanitaria el trabajo en salud mental con los proyectos de la prevención del suicidio etcétera sin duda

y la colaboración del resto de instituciones desde la perspectiva de salud en todas las políticas que es el mejor modelo para intervenir sobre las causas de las causas y disminuir las desigualdades

lehendakari consejeros vamos a seguir hablando de ope de ópera vamos berbotsa y vamos hacerlo porque bueno

recientemente en un medio de comunicación un análisis después

la sesenta y seis edición de la temporada de la abao

relevante o que la justificaba de alguna manera y decía

importante periódico vasco quieren o no que haya opera y decía que el final de la temporada vuelve a interpelar

en su gasto cultural bueno eso no lo decíamos nosotros eso lo hemos visto en los medios de comunicación durante estas últimas semanas en algún pleno de control también hemos podido hablar de museos con el consejero de lectura de libros

hablaremos de archivos pero hoy toca la ópera hoy toca la música una de las referencias culturales más importantes

decenas de colaboradores primera calidad musical del mundo turismo

personas vinculadas de una u otra manera ciento noventa centros educativos beneficiarios desarrollo turístico de bilbao importantísimo y económico bueno eso forma parte de esa realidad

vuelvo a decir recientemente esos medios de comunicación y después de ver también la última carta en la memoria del déficit que lleva arrastrando estructuralmente la abao bueno se ponía de manifiesto por parte también de la dirección

eco de ella en relación con las

nosotros cómo valora la insuficiente atención económica del gobierno vasco y de las administraciones públicas vascas

a la vista de las informaciones muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

el gobierno vasco es la única institución pública del estado español que ha mantenido un apoyo sostenido al festival de la opera

ese artículo de opinión al que usted se ha referido yo comparto con usted que el festival de ópera de bilbao es una cita cultural relevante y esa es la razón

se ha mantenido durante el tiempo una característica especial del festival es que a diferencia de los otros festivales de ópera del estado español la asociación bilbaína de amigos de la ópera es una iniciativa privada surgida de la sociedad vizcaína y como bien ha dicho usted cuenta hoy con aproximadamente cuatro mil quinientos socios con una gestión seria

comprobar en la información que tienen expuesta al público y con un programa artístico interesante y de calidad el carácter privado de esta iniciativa

el palacio de las artes de valencia el teatro de la maestranza de sevilla

de oviedo todas ellas de iniciativa y financiación mayoritariamente pública

porque además contamos con un espacio público como es el palacio euskaduna y con dos orquestas públicas como son la orquesta sinfónica de euskadi y la orquesta sinfónica de bilbao

por la calidad de su programación por la profesionalidad de su gestión

el nivel de autofinanciación del festival supera el setenta y seis por ciento con un presupuesto en su última edición de seis coma siete millónes de euros lejos

del liceo y las aportaciones públicas alcanzan la cifra de uno coma cinco millónes de euros algo más del veintitrés por ciento de sus ingresos estos últimos años

que se ha traducido en una menor aportación de algunas administraciones públicas

y entradas vendidas y el gobierno vasco es la única institución que ha mantenido su apoyo anual

gracias presidente gracias consejero bien el artículo citaba también que

la misma pregunta ineludible quieren o no las instituciones vascas que siga habiendo opera en bilbao tras varios años de erosión en los fondos propios de la abao en un esfuerzo

en la jerarquía de su gasto cultural esto es la pregunta que desde luego desarrolla esa llamada de atención que nosotros veíamos en una crítica de un experto en cultura por parte del medio de comunicación y sobre todo conociendo el ámbito al que se refería a mí sí me gustaría saber

porque yo creo que esto la valoración es que ustedes efectivamente

muchísimo menos muchísimo menos y eso llama la atención quizá ese mix de

el artículo apela a las dos o más a una pero en cualquier caso habla de las instituciones vascas a mí sí me gustaría saber si la organización si

ha manifestado al gobierno vasco también su preocupación en este sentido es decir repito antes el propio presidente de la abao

se hace referencia al artículo o sea que en ese sentido me gustaría saber si esa preocupación se ha transmitido al gobierno vasco

señor barrio yo creo que tenemos un sistema público privado montado para la opera que funciona razonablemente bien y las decisiones principales creo que corresponden a la propia asociación de amigos de la opera de bilbao

el teatro real para una población de seis millónes de personas programa trece títulos de ópera el liceo para una población de cinco millónes trece títulos

para una población de un millón de personas programa

es razonable o no no lo sé con respecto a las otras instituciones vascas su partido tiene representación en otros ámbitos territoriales y puede plantear allí la pregunta correspondiente

en la consideración del gobierno español especialmente cuando ustedes han estado gobernando en la misma que ha pasado de aportar tres millónes de euros en el año dos mil ocho a quinientos diecisiete mil del año dos mil diecisiete eskerrik asko